eta baita ere ikertzeko ahalmena hobetuz en el sentido de dar eficacia al instituto consideramos positivo que se asuma la necesidad

y datos verídicos mediante trabajos de investigación y estudio entendemos que el instituto capacidad para realizar estas investigaciones de manera absolutamente imparcial y objetiva acreditando los cientos y miles de vulneraciones de derechos humanos que aún permanecen sin desvelarse o de las cuales existe un conocimiento insuficiente sesgado o erróneo

técnico que pueda desarrollar este trabajo de manera imparcial y rigurosa nos congratulamos por lo tanto de que se incorpore esta enmienda

al terreno de vulneraciones o violencias que pretende abarcar el instituto nos parece adecuado tomar en consideración todas aquellas violencias de carácter político

desde el alzamiento fascista hasta hoy en día hasta la actualidad estamos de acuerdo pues con el período que se somete al entendimiento de este instituto

de manera inclusiva sin categorizaciones no entendemos de esos discursos

de equiparación de víctimas de prioridades imperativas hacia algunas o de prioridades por decreto de sus derechos los principios internacionales lo establecen de manera

a igualdad de vulneración isiltasuna mesedez igualdad de derecho de las víctimas

dictamen la mención al principio de igualdad de derechos de las víctimas de idéntica categoría de vulneración creemos que es una importante aportación un principio internacional que hace un enmarque básico para promover estos derechos que asisten a toda víctima

reparación y memoria sin embargo esta mención se contradice con otras dos cuestiones que hemos intentado también corregir por medio de enmiendas que someteremos ahora a votación

consideramos que no es aceptable esta terminología que se utiliza para designar las distintas violencias se huye de términos objetivos para emplear connotativos con una carga emocional y con una intencionalidad política evidente son términos que no resultan para nada

en términos de mera respuesta todo estaba justificado para enfrentarse a eta si bien en ocasiones

según en ocasiones podía resultar ilícito guerrilleros de cristo rey

practicaron contra terrorismo ilícito contra terrorismo ilegal no aunque lleven en su nombre el término o aunque así se hayan querido justificar fue otra cosa

no fueron otra cosa a menos que ahora se quieran justificar se quieran explicar se quieran contextualizar en esa siempre todopoderosa

en esa lucha contra eta se ha perseguido la actividad política social cultural se han cerrado

algo que ha sido también denunciado en este mismo parlamento se calificarán estos hechos también como contra terrorismo ilícito o es que resultó lícito les quiero lanzar hoy una reflexión vamos a homenajear después

sin duda aquel hecho se puede calificar de mil maneras

de contraterrorismo ilícito hoy les pido que reflexionen sobre ello proposatu genuen beste izendapen bat

dijimos que este país necesita una institución para la memoria la convivencia y los derechos humanos no esta pues adolece de importantes

a la abstención dijimos que trabajaríamos de manera constructiva

buenos días gracias señora presidenta señoras y señores parlamentarios lehendakari consejero

mi grupo en relación con la presente proposición de ley mantiene las enmiendas que no fueron aceptadas en el trámite de ponencia y de comisión tras la toma en consideración de la iniciativa hace más de un año

el periodo de hibernación que sufrió y el trámite de ponencia y la posterior comisión parlamentaria

con las mismas claves del inicio aquellas que se debatieron

y que en nombre de mi grupo defendió el señor sémper

queremos decir que el núcleo de las enmiendas que mantenemos y que son el fundamento del fondo de nuestra consideración

de un llamado instituto de la convivencia y de la memoria se mantienen como al principio nosotros el grupo popular manifiesta que su voto va a ser en contra de la creación de este instituto tal y como está concebido y tal y como se va a regular inminente ley está claro que se nos han aprobado diecinueve enmiendas y tres se han sometido a transacción

enmiendas presentadas cuarenta y uno que aglutinan la orientación que el grupo popular pretendía dar al instituto no han sido asumidas es decir el instituto queda tal y como fue concebido y en ese sentido pensamos que las enmiendas aceptadas

mejoraban clarifican dan corrección legislativa coherencia a un texto

para qué el fondo sobre qué bases de la concepción del instituto

nuestra enmienda a la totalidad por decirlo así sigue como al principio nuestras enmiendas trataban de enfocar

hacia la memoria y el trabajo activo por las víctimas del terrorismo en este país nosotros no vemos la utilidad ni la conveniencia de un instituto que aborde mezclándolas

realidades democráticas con características orígenes y consecuencias y víctimas muy distintas

y nadie nos ha sabido explicar por qué mezclar en un instituto de trabajo realidades como la guerra civil y el franquismo con las expresiones terroristas ocurridas en la democracia básicamente con el terrorismo de eta

ultras no comprendemos qué se pretende con esa mezcla de realidades si no es conformar

que diluya el esfuerzo que debe hacer aún la sociedad con las víctimas del terrorismo

la construcción de un relato en ese sentido la situación de no disolución de eta y su presencia aún como un pretendido e histriónico agente político

por superar esa fase por cierto qué gran sarcasmo en relación con la convivencia y los derechos humanos prisionera aún de sus nexos de unión con eta hace que entendamos y por eso el sentido de nuestras enmiendas la proposición de ley que era una prioridad euskadi tuviera que poner a día de hoy en el frontispicio de su reconocimiento democrático a las víctimas del terrorismo a las víctimas de eta y no ocurre eso con la creación de ese instituto

el ejemplo más claro es que todos en este parlamento condenamos y rechazamos los crímenes de la guerra civil todos condenamos y rechazamos la dictadura franquista y cualquier otra y sus expresiones totalitarias pero todos aquí no condenan a eta ni condenan la dictadura quiso imponer estas asignaturas pendientes inhabilitan a nuestro juicio ese afán de mezclar a las víctimas de eta a las víctimas del terrorismo y sus necesidades democráticas con otras realidades brutales y de gran vulneración de derechos y libertades

que se quiera profundizar en la incomprensible senda de la teoría del conflicto desde nuestro análisis este instituto es un paso más en la obsesiva consideración de que todo está interrelacionado y eso no es verdad nuestras enmiendas quieren enfocar el tema de una manera que todos ustedes conocen

explicado abundantemente pretendíamos que el instituto de la memoria y de la convivencia como dice nuestra enmienda

el instituto de la memoria y de la convivencia tiene por finalidad la participación en el diseño promoción desarrollo y ejecución de la política pública relativa

de aquellas personas que sufren o hayan sufrido la acción terrorista o la acción de personas que integradas en bandas o en grupos armados actuarán con la finalidad

desde luego además de esta enmienda otras enmiendas las que se dijese que el instituto velará por preservación desarrollo difusión del patrimonio colectivo

de la defensa de los principios y valores que sustenta la convivencia democrática y que encuentra en el testimonio de las víctimas del terrorismo parte insustituible de ese patrimonio o esa otra enmienda que quería que este instituto impulsará la difusión promoción defensa del derecho a la memoria de las víctimas del terrorismo o aquella que cuando habla de conservación desarrollando la labor de preservar el patrimonio de la memoria de las víctimas del terrorismo con la creación y mantenimiento de fondos de información e inventarios

sean bienes espacios físicos entornos sociales u otros que sirvan de identificación y conocimiento social o aquella que en relación con la formación impulsando la educación para la paz y los derechos humanos así como la promoción de los valores democráticos

en todos los niveles entre la comunidad educativa contando con el

de las víctimas del terrorismo y muchas más en relación con la consulta de los informes y las funciones de ese instituto es decir

que nosotros presentábamos y en coherencia con esta inmensa mayoría de las enmiendas no aceptadas

además ha sido una iniciativa parlamentaria en las que las víctimas del terrorismo no se han visto mayoritariamente reflejadas las principales organizaciones de víctimas del terrorismo y de víctimas de eta no comparten las claves en las que este texto

nosotros hemos entendido cuáles son esas mismas claves además este instituto

en estas claves entendemos que el esfuerzo debía de hacerse sobre la realidad sobre una realidad que todos hemos conocido y casi todos hemos sufrido además y no en esa mezcla

con anterioridad y sin embargo se conforma esta primera institución sobre la consagración de la confrontación

por qué a la hora de leer la exposición de motivos de esta proposición de ley da la sensación de que la guerra civil

las víctimas de eta las víctimas del terrorismo todo está interrelacionado por qué da esa sensación mire a nosotros no nos gusta esa sensación y por ello nos oponemos a esta iniciativa yo ya

tal vez otro instituto una vez creado

tal vez otro instituto sobre las bases del estudio de los derechos humanos el ligado a la universidad podría ser pero desde luego

y diferenciadas que se nos presenta en esta proposición de ley desde luego no pensamos que tiene utilidad y no pensamos que acierta ni pensamos que es

nuestras enmiendas pretendían esa finalidad honrar en ese primer en este primer gran esfuerzo institucional a las víctimas del terrorismo

gracias señora presidenta señorías hoy culminamos en este pleno

un largo camino de diálogo debate y consenso

crear el instituto de la memoria la convivencia y los derechos humanos yo creo que es necesario recordar que la creación del instituto de la memoria la convivencia y los derechos humanos que hoy vamos a aprobar hay que enmarcarlo siendo un instrumento muy importante en una política integral de memoria convivencia y derechos humanos

con gobierno socialista de la que forman parte es verdad este proyecto de instituto de la memoria de la convivencia y los derechos humanos pero también

el día de la memoria los actos de homenaje y reconocimiento a las víctimas del terrorismo la presencia de las víctimas del terrorismo en las aulas

los encuentros entre víctimas y victimarios la vía nanclares por cierto una vía que como se está comprobando recientemente está dando sus frutos y pone de manifiesto que es el camino que tienen que recorrer si los presos hacen sus deberes para reinsertarse en la sociedad

que hoy vamos a aprobar también tiene

hemos aprobado y tiene que ser un instrumento para primero recordar el dolor el sufrimiento el daño que el terrorismo ha causado en nuestra sociedad todos los terrorismos

y recoja con toda claridad que las actividades terroristas no han tenido no tienen y nunca tendrán justificación que la defensa de los valores éticos y democráticos que la memoria sustentada en verdad y justicia la defensa de los derechos humanos el respeto a las reglas de juego aunque sea para cambiar estas reglas de juego son imprescindibles para construir el futuro de una sociedad decente que es necesario en este caso dejar claro algunas cosas en relación con el proyecto no estamos impulsando un gran memorial con un edificio emblemático estamos impulsando un organismo público que no tiene por qué tener ni siquiera

que dé cabida a sus actividades estamos impulsando insisto un organismo público tal como se recoge en la exposición de motivos y en los artículos de la ley que tiene objetivos muy claros y que

dejarse también recogido como se recoge y aclararlo aquí también hoy que no equipara ni acontecimientos dramáticos ni víctimas

desde luego deja muy claro que la memoria no tiene que utilizarse para equiparar acontecimientos que por supuesto este instituto ni la memoria va a servir para

el instituto es especialmente necesario en este país que ha tenido muchos acontecimientos traumáticos que es necesario recordar porque tenemos la obligación de recordar

que el totalitarismo y el terrorismo ha causado en euskadi para evitar que en el futuro nadie tenga la tentación de volver a utilizar el terrorismo y la violencia para defender sus posiciones

franquista y es necesario también recordar y denunciar igualmente la monstruosidad que representa eta y sus acciones terroristas que sembró de muertos a este país también en plena democracia y tenemos que recordar también y denunciar claro que sí a quienes

de tomarse la justicia por su mano cuestionando la legitimidad del estado tenemos que recordar todo lo que ha ocurrido insisto para que nadie tenga la tentación de volver a coger un arma para eliminar al diferente o defender

apoyándose en la violencia terrorista tenemos que asentar la convivencia sobre bases éticas y democráticas sólidas y este proyecto

diluye responsabilidades ni mezcla acontecimientos todo lo contrario se recoge expresamente en la exposición de motivos y en el articulado de la ley todo lo contrario

va a permitir que alguien pretenda diluir responsabilidades y no asuma las que tienen que asumir por haber cometido actos terroristas o haber dado amparo y justificación a la violencia terrorista y es precisamente por esto por lo que

introducir en el articulado y el contenido de la ley eh bildu por lo que vamos a votar en contra de sus enmiendas y

los gal la triple a fueron organizaciones terroristas

condenamos rechazamos repudiamos todas las actividades terroristas de todos los grupos terroristas los socialistas vascos condenamos rechazamos

o de muguruza como rechazamos condenamos repudiamos los atentados terroristas de eta los cientos centenares de atentados de eta

el chantaje la amenaza a la que eta sometió a miles de ciudadanos en el país vasco y si usted tendría la valentía y su grupo de subir a esta tribuna la réplica

los actos terroristas de eta mucho habremos avanzado en este país también votaremos en contra de las enmiendas que presenta el partido popular lamento decirlo así porque creo que no han entendido nada ustedes pretenden simplemente que el instituto de la memoria y la convivencia sea una réplica o dicho de otra forma duplicar los esfuerzos que tiene que atender y las políticas que tiene que atender el memorial de víctimas del terrorismo

nosotros estamos de acuerdo con ustedes que es prioritario que exista un instrumento como el memorial de víctimas del terrorismo para atender recordar a las víctimas del terrorismo y hacer políticas que todos compartimos pero en fin

a su gobierno porque me reconocerán que llevan un año y pico perdido casi dos años para ser más exacto y por lo tanto si es prioritario que tengamos un memorial para las víctimas del terrorismo en fin adopten las medidas para recuperar el tiempo perdido y que pueda ser una realidad lo antes posible y mire expresamente la ley si se lee con detenimiento

ni por supuesto equipara víctimas en todo caso yo espero que el instituto sea un instrumento más insisto en la política integral de memoria y convivencia

para finalizar permítame señora presidenta una cuestión que me parece importante yo espero que el instituto de la memoria la convivencia y los derechos humanos también sirva para que hablemos de memoria convivencia derechos humanos y menos de paz porque señorías paz es lo que estamos disfrutando paz es lo que hemos conquistado ya

andar por las calles sin escolta no sufrir amenazas extorsión

paz es que todos puedan defender en democracia sus proyectos políticos siempre que se respeten las reglas de juego incluso como he dicho para cambiar estas reglas de juego

hacer política de memoria sobre verdad y justicia y asentar definitivamente la convivencia en euskadi muchas gracias

las enmiendas planteadas por los grupos de eh bildu y popular se podría dividir en tres grandes bloques

al ser propio del instituto las enmiendas que se orientan a la modificación del modelo de estructuración del mismo y las enmiendas de detalle que hacen distintas aportaciones a unos y otros aspectos puntuales del texto en la proposición de ley sobre las enmiendas de los dos primeros bloques

porque desnaturalizaban sustancialmente el ser del mismo los objetivos y la naturaleza o estructura del instituto sobre las del tercer bloque se ha llegado

y la transacción de otras siete respecto a las enmiendas al eje definitorio del instituto del grupo euskal herria bildu estas

en un multicentro en un instituto multitarea en base a estas enmiendas el centro sería

pero tanto como eso o más observatorio de derechos humanos comisión de la verdad

y algunas otras cosas más al margen que una caracterización de este estilo no es operativamente viable

de eh bildu es la necesidad de difuminar la parte específica de memoria que afecta a la historia de eta en una multiplicidad de funciones y referencias que permita compensar unas con otras y esto señorías no es aceptable desde el punto de vista de los principios

y en cualquier caso este bloque de enmiendas de aceptarse desdibujaría la misión principal del instituto con las enmiendas del grupo popular por el contrario se da la paradoja de que mientras eh bildu orienta sus enmiendas a difuminar la parte de memoria que afecta a eta

de las víctimas del terrorismo y más concretamente de las víctimas del terrorismo de eta un buen número de enmiendas se limitan a añadir a la palabra memoria la acotación de las víctimas del terrorismo al parecer en el concepto de política pública de memoria del partido popular solo entra la historia de eta al margen de ello

es merecedor de consideración o por lo menos su atención debe esperar a que se cumpla primero este otro concepto que ellos plantean esto señorías tampoco es aceptable desde el punto de vista de los principios y contenidos de los acuerdos del parlamento vasco en materia de paz y convivencia

como por ejemplo las conclusiones de la ponencia de paz y convivencia de la legislatura pasada en todo caso lo que más poderosamente llama la atención es que estas enmiendas olvidan como decía el señor ares la totalidad la globalidad de la política pública de memoria en su conjunto olvidan además que paralelamente se está impulsando o debería estar impulsando el gobierno del partido popular

un centro memorial de las víctimas del terrorismo en vitoria las enmiendas del grupo popular por tanto de aprobarse llevarían a la creación de dos centros iguales dentro de la comunidad autónoma

y que desde luego casa poco con las políticas de austeridad que el propio partido popular defiende respecto al modelo y estructura del instituto el modelo que plantea la ley se parecería por poner un ejemplo al modelo de emakunde de modo que el instituto

del gobierno vasco como un organismo autónomo dependiente del mismo pero con una amplia representación de la sociedad civil en su consejo de dirección eh bildu por el contrario propone un modelo

sin presidente y su director sería elegido por el parlamento vasco

y se trata de optar los modelos estructurados en base a la elección del parlamento no están exentos de politización partidaria y de cálculos o bloqueos que afectan a su funcionamiento diario buen ejemplo de ello se encuentra en todas las instituciones españolas que dependen de mayorías parlamentarias como por ejemplo el consejo general del poder judicial

la ley apuesta por hacer que el gobierno vasco asuma el compromiso y la responsabilidad

integrar todos los acontecimientos traumáticos que supusieron vulneración sostenida de derechos humanos y promover el diálogo y la participación entre memorias ese es el objetivo y no la justificación de ningún tipo de teoría del conflicto esto es lo verdaderamente relevante y este es el compromiso que ha de asumir a partir de este momento también el gobierno vasco

en base a la ley la columna vertebral del instituto es el impulso de una política pública de memoria la clave es la memoria es la columna vertebral y el eje definitorio esto es lo que se desprende del contenido de la exposición de motivos y de las partes del articulado más descriptivas de su finalidad y sus funciones y contraterrorismo ilícito

no supone minusvaloración de su gravedad y mucho menos cualquier tentación de justificación

han supuesto violaciones graves de los derechos humanos el concepto define y afirma la existencia de un contexto criminológico

y lo más importante también define un ámbito victimológico propio que permite reconocer a todas sus víctimas bajo el principio de igualdad y no discriminación con respecto a otras víctimas de violaciones de derechos humanos

pero su misión se centrará específicamente en la memoria lógicamente la política pública de memoria tiene como objetivo la convivencia democrática y lógicamente también

una política pública de memoria integral y específica es lo que las enmiendas no admitidas de eh bildu y del pp tratan de evitar desde ángulos opuestos

y en el caso del pp para que lo integral de todas las vulneraciones de derechos humanos quede oculto destacando solo el terrorismo de eta

compromiso por integrar en la política pública de memoria todos los acontecimientos traumáticos que supusieron vulneración sostenida de los derechos humanos sin excluir ninguno

por no concebir la política pública de memoria como la imposición de un relato sino como la promoción del diálogo y la participación entre memorias democráticas con un solo límite no legitimar ninguna forma de conculcación de derechos humanos pasada presente o futura

una paz con memoria como la mejor garantía de que hechos como los sufridos no vuelvan a repetirse jamás que jamás nadie pueda invocar un objetivo político ni la razón de estado

está por encima de cualquiera de ellos eskerrik asko eskerrik asko

mezclar realidades equiparar acontecimientos tengo entendido que este año el premio

y quiero preguntar si en esta iniciativa quedan difuminados equilibrados diluidos esas realidades creo que es

creo que es un ejemplo de no categorización de violencias ni categorización de los derechos que deben de asistir a las víctimas no

patrimonializar esta iniciativa no quiero que con mi posición se entienda que la quiero patrimonializar

sobre la mesa la necesidad de que se reconozcan absolutamente

todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos iturrate jauna esaten duzu

institutu honen egitekoa tengo que anunciar

una proposición no de ley para que este instituto asuma como primera tarea verificar los extremos que aparecen en aquel informe base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco mil novecientos sesenta dos mil trece realizado a solicitud del gobierno por cuatro expertos

que representan las cuatro sensibilidades políticas vascas queremos que se tenga en cuenta este informe tanto en las categorizaciones los términos que dispone como en la extensión de la violencia que incluye espero con el apoyo del resto de los grupos parlamentarios en esta proposición no de ley que vamos a presentar porque ciertamente como se ha dicho en más de una ocasión este proyecto

venía de la anterior legislatura dejémosla atrás

con las fuerzas y con las energías de la presente legislatura eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna euskal talde popularraren ordezkaria

en las claves que hemos mantenido en relación con las necesidades que tiene este país el señor ares me dice que yo no que no hemos entendido nada mire señor ares

que el primer gran esfuerzo institucional en este país tenía que ser con las víctimas del terrorismo

independientemente de la responsabilidades de los demás independiente de otros esfuerzos institucionales

el de este parlamento en este país ese debía ser nuestro esfuerzo y eso es lo que hemos entendido y señor ares yo creo que usted

yo creo sinceramente que ustedes se han confundido en relación con esta cuestión han creado un recurso político

han creado un recurso político a favor de la teoría

me gustaría no haberlo tenido que decir pero se han equivocado se han confundido en relación con esta cuestión nosotros hemos sido muy claros en nuestras enmiendas y efectivamente luego vamos a reconocer vamos a recordar

que ha asesinado en democracia y ahí está la memoria en las víctimas de eta en las víctimas del terrorismo

las claves donde tendríamos que haber puesto la prioridad en relación de lo qué es esa construcción de un instituto de la convivencia y de la memoria el país vasco

no incluirlas en un marco tan amplio tan heterogéneo tan confuso como el que ustedes nos proponen este instituto señor ares no busca deslegitimar a eta

está deslegitimado ya pero hay que trabajar todavía en la deslegitimación de eta señor ares para el planteamiento del instituto que ustedes nos presentan había que dar unos pasos previos que aún no se han dado no se han dado esos pasos previos señor ares los crímenes de la guerra civil la dictadura franquista los crímenes del gal del batallón vasco español los crímenes ultras están señor ares señor iturrate

pero los crímenes de eta la propia eta qué falta todavía señor ares señor iturrate qué falta todavía en relación con esas necesidades democráticas usted me hablaba de la ponencia de que podíamos ser contradictorios con la ponencia que hizo

al revés nosotros tratamos con este esfuerzo que hemos hecho de apuntalar esas claves de la ponencia de deslegitimar de dar pasos por

a eta pasos que todos no han dado vuelvo a decir el resto de realidades brutales

se han deslegitimado el que falta aún no es decir la deslegitimación de eta por parte de parte de esta cámara todavía no y eso es un paso importante un paso previo decía nuestro portavoz en el debate de toma en consideración de esta iniciativa algo muy claro

que creen que asesinar tiene ha tenido justificación y hay vascos que creen que eta tiene justificación y que no tiene que disolverse y que pedir perdón

previa que desde luego no figura en lo que son las consideraciones que debiéramos tener todos señor ares este es un recurso político a favor de la teoría del conflicto nuestras enmiendas han tratado de neutralizarlo han tratado de atacarlo pero esto es así

pero he entendido lo suficiente muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko ares jauna zurea da hitza

gracias señora presidenta señor barrio yo comparto con usted que el primer gran esfuerzo que tendríamos que haber hecho era que el memorial de las víctimas del terrorismo estuviera

y yo soy consecuente porque precisamente porque pensaba que ese era el objetivo nada más constituirse el gobierno del pp

y ustedes reconózcamelo desde ese momento han perdido al menos dos años

la mejor forma de saber cuáles son los objetivos y los fines que tiene que perseguir el instituto de la memoria de la convivencia y de los derechos humanos

y en todo caso escucharlos a los promotores del mismo porque los fines de ese instituto no son los que dice o los que pretende el señor arzuaga y eh bildu precisamente porque no lo son

y precisamente porque no estamos de acuerdo con lo que ellos plantean

en fin escúchenos a los demás no busque justificaciones para mantener su posición porque

que la memoria no tiene que servir ni para rescribir la historia ni por supuesto puede ser justificativa para equiparar acontecimientos ni víctimas ni mucho menos para justificar actividades o actos terroristas y mire

nosotros no pretendemos ocultar nada y como usted ha hablado de hipócrita

es la actitud suya y de su grupo que no acaban de hacer lo que todo el mundo está esperando que haga

yo lamento que ustedes no tengan la valentía para hacer lo que los demás hacemos y lo que la inmensa mayoría de la sociedad espera es que digan algo tan claro como que asumen que su apoyo y justificación a la violencia terrorista durante tantos años fue una equivocación y fue un error

y que como todos los demás dicen que todas las actividades terroristas todas

son rechazables y condenables el problema es que ustedes no lo hacen y por lo tanto pretenden justificar su historia y la historia de eta con discursos

para llegar a acuerdos con los demás nuevas palabras no trabajen en el diccionario trabajen

y ahí sí seguro que nos podemos encontrar no rebuscando en el diccionario porque mire las víctimas

ni todas son iguales porque no es igual no puede ser igual quien ustedes califican de víctima porque murió conduciendo un coche

no puede ser igual esa víctima que ustedes califican como víctima aquella que fue

son radicalmente diferentes los acontecimiento y los hechos

y cuando empiecen a entender esto estaremos también en el camino

quien tomó la decisión voluntaria de convertirse en un terrorista para asesinar y cometer actividades terroristas

para consolidar esa democracia para todos para consolidar la pluralidad la libertad en este país somos radicalmente diferentes

y construir la convivencia juntos también incluso si quiere hasta con un poco de olvido pero

no van a reescribir la historia y ustedes tienen muchos deberes que hacer que todavía no han hecho háganlos

me sorprende que utilice usted como ejemplo de sus políticas de memoria la iniciativa

que nace en la época y con el visto bueno del señor balza consejero de entonces de interior

con el señor ares consejero también de interior posteriormente y miembro del partido socialista ambos impulsores de la ley

porque se trata precisamente de un ejemplo de los esfuerzos de la paz y convivencia y de la forma de entender la lucha por la

nuestro concepto de entender y de construir y ese exactamente responde

es una parte más una pata más de las mismas políticas de memoria

y nos pregunta si tenemos miedo a la verdad ningún miedo a la verdad

este gobierno ha dado ejemplos claros de que no tiene ningún miedo a la verdad ha puesto sobre la mesa un informe sobre violaciones de derechos humanos al que usted ha hecho referencia ha encargado un informe

ha encargado un informe sobre atentados no esclarecidos atentados de eta no esclarecidos que se presentará probablemente la semana que viene qué ha hecho

salvo justificar durante años la existencia de eta no será que a usted no le preocupa el término contraterrorismos ilícitos porque según

todos los contraterrorismos eran ilícitos hasta los que eran lícitos

que contra eta había que luchar desde la legalidad desde el respeto a los principios

no será ese el problema ningún miedo a la verdad en todo caso miedo a la manipulación de la verdad

pretende hacer y señor barrio decir que esta ley justifica la teoría del conflicto es simplemente una falacia una falacia una mentira que ni a fuerza de repetirla continuamente como ustedes hacen al más puro estilo del manual de goebbels se va a convertir en realidad ni para ustedes mismos pero además no no no lo es ustedes la repiten pero no se la creen pero además le voy a decir una cosa más señor barrio cada vez que lo repiten cada vez que repiten ustedes ese argumento

agrediendo injusta dolorosa y gratuitamente a todas las víctimas inocentes que han sufrido vulneraciones graves de los derechos humanos en euskadi por parte de lo que la ley define como contraterrorismos ilícitos y deberían ustedes que

y privadamente defienden los derechos de las víctimas a la memoria a la verdad a la justicia a la reparación deberían ustedes cuidar de ofender de esa manera tan reiterada

no se trata solamente de hacer una condena genérica como la que muchas veces denunciamos en la izquierda abertzale y a la que reclamamos palabras más claras ya que usted

qué opina usted de que el señor galindo el señor elorriaga o todos los condenados por el secuestro el asesinato y la tortura

no cumpliesen ni una décima parte de su condena qué opina usted lo denuncia públicamente hágalo qué opina usted de que ningún preso del gal

del batallón vasco español haya cumplido más que una ínfima parte en el mejor de los casos de su condena qué opina usted qué le parece

a la normalización política en este país cree usted que hay que trabajar en la memoria de eso o no cree qué opina usted de las sentencias

al estado español al reino de españa por no investigar las torturas convenientemente qué opina usted

que debemos exigir al estado a los gobiernos y al poder judicial pero también a los gobiernos una actitud más diligente

al gobierno del señor rajoy mire usted para terminar

en este mismo parlamento cuando decía que la memoria no debe servir para quedarnos paralizados mirando hacia atrás

sino para repensar y construir juntos el futuro y recientemente

decía que la memoria es sanadora y como nosotros queremos avanzar y construir juntos juntos entre todos una paz con memoria y un futuro

es por lo que vamos a votar en contra de las enmiendas y a favor del texto del dictamen nada más gracias eskerrik asko iturrate jauna eztabaida

hemos votado que no a la creación de este instituto

explicando desde el debate de la toma en consideración de la proposición de ley que nos presentaron en su momento el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

se mezcla el terrorismo de eta con otros hechos y a las víctimas del terrorismo con otras víctimas se diluye el terrorismo de eta en un océano de maldades

político ya saben la historia de que aquí hubo algo así como dos bandos enfrentados cada uno de los cuales tuvo sus propias víctimas y donde el terrorismo de eta es simplemente una violencia más entre todas ellas se equiparan violencias y víctimas y puede servir para que eta y los que hoy siguen sin condenarla justifiquen su trayectoria horregatik ezetz esan dugu

bultzatzen delako más que un instituto en euskadi necesitamos voluntad política para hacer memoria

utilizar el lenguaje apropiado para llamar a las cosas por su nombre defender la verdad y hacer justicia hori da euskadin behar duguna memoria egiteko

borondate politikoa egia gogoratzeko eta kontatzeko esa es por tanto la condición indispensable contar la verdad y pondré un ejemplo

pues bien ni uno solo de los que intervinieron en la ceremonia

fue asesinado por eta recordó los hechos ocurridos en esa ceremonia nadie nombro a eta el lehendakari el lehendakari recordó en su intervención la necesidad de hacer memoria pero no citó en ningún momento a la banda terrorista nadie osó decir que joxe mari korta fue asesinado

es un simple ejemplo que demuestra en fin la cobardía moral de una parte de la sociedad que lejos de llamar a las cosas por su nombre prefiere dulcificarlo todo y evitar calificativos palabras y hechos mala forma de hacer memoria si no se recuerdan los hecho ocurridos tal como sucedieron

marcadas por la violencia y se cita la guerra civil la dictadura franquista el terrorismo de eta

y desde luego será utilizado por algunos para seguir justificando

y puesto que esta ley ya ha sido aprobada y con ánimo constructivo pedimos que de ahora en adelante no se manipule la historia

contra la segundo república contra el gobierno legítimo de la

lo cual llevo en españa a la guerra civil fratricida que produjo

esta guerra civil no fue una guerra de españa contra euskadi como han pretendido vendernos algunos sino

con todo lo que ello implica de persecución de las libertades civiles y democráticas durante la dictadura franquista no hubo demasiados antifranquistas y desde luego

hoy día hay muchos más antifranquistas que los que hubo entonces y muchos de los que hoy lo son o dicen serlo cuando debieron serlo realmente no lo fueron

pero una grandísima parte de sus asesinatos los cometió

baste recordar que eta asesinó a cuarenta y cinco personas durante la dictadura a ochenta y nueve durante la transición y a setecientos veinticuatro durante la democracia

condenamos sin paliativos ni disimulos mientras que eta contó durante décadas con el apoyo político y social de una parte de la sociedad vasca

una parte de la sociedad vasca se mantuvo silente durante demasiados años y a parte de los que la sostuvieron con su discurso y con sus actos hubo demasiados que miraron para otro lado hoy día todos los demócratas condenamos el golpe fascista la dictadura franquista

no todos condenan a eta en este mismo parlamento hay un grupo que siguen condenar a eta que no le exige que desaparezca incondicional y definitivamente y que no le exige las armas el problema fundamental y distintivo que ha tenido la sociedad vasca en las últimas décadas ha sido el terrorismo de eta y la decisión de una parte de esa sociedad

desatendidas y parcialmente olvidadas por las instituciones y exigen memoria verdad reparación y justicia es necesario atenderlas y desde luego aclarar los crímenes cometidos por eta hoy de resolución más de trescientos esta es la tarea pendiente que tiene la sociedad vasca y la principal atender a esas víctimas del terrorismo y hacer justicia en fin voy terminando presidenta estos son lo hecho ocurridos

y nietos como decía antes más que un instituto necesitamos sobre todo voluntad política y valentía para hacer memoria recordar los hechos ocurridos tal como se produjeron

cumplir la ley respetar el estado de derecho deslegitimar a eta defender la verdad y hacer justicia nosotros nos comprometemos a ello

termino en medio minuto presidenta con su permiso en el dos mil siete

los que hoy son considerados terroristas puede que mañana no lo sean depende de quién gane la batalla política efectivamente unos pretenden manipular la historia y blanquear la suya propia y otros queremos recordarla tal como fue nosotros queremos contarla y recordarla tal como fue y estamos además dispuestos a ganar

hemos presentado una propuesta de modificación de la ley de principios ordenadores de la hacienda general del país vasco y es una reforma la que proponemos pequeña pero importante a efectos de transparencia

y la transparencia que supuestamente todos los gobiernos y todas las administraciones quieren tener con los ciudadanos y en concreto

a las subvenciones que concede el gobierno vasco dichas subvenciones están reguladas en el artículo cuarenta y nueve

de la propia ley y ese artículo regula las subvenciones que evidentemente da el gobierno vasco y en el

de concurrencia y objetividad que se publicarán en el boletín oficial del país vasco las normas que las regulan las ayudas las subvenciones

y solo hay dos excepciones a esa digamos transparencia a esa publicación en el boletín oficial de las subvenciones que da el gobierno vasco hay dos excepciones una es cuando la subvención figura nominalmente en los presupuestos como vienen en el apartado seis y luego hay otra excepción

a propuesta del consejero del departamento interesado concede de forma directa a estas subvenciones no se le da de aplicación los puntos anteriores es decir la obligatoriedad de publicarse en el boletín oficial aquí en el gobierno de forma directa concede una subvención sin concurrencia sin normativas etcétera etcétera por lo tanto parece que en principio

transparencia debieran estar también publicadas

este tipo de subvenciones nosotros lo hemos planteado porque en el último informe del tribunal de cuentas esta es una recomendación que hacía el tribunal de cuentas nos sorprendió que un parlamentario dijera allí que no hacía falta y digo que nos sorprendió porque

porque estas subvenciones como bien he establecido

en el punto nueve pues el gobierno dará cuenta trimestralmente de este tipo de subvenciones a la comisión de hacienda del parlamento vasco y con eso ya supuestamente están cumplidos todos los criterios de transparencia a efectos

una razón suficiente esa y evidentemente hicimos la propuesta que hoy se está viendo aquí y la hicimos exactamente

el gobierno nos ha mandado su criterio diciendo que

esta propuesta que nosotros hacemos por lo tanto espero que el grupo nacionalista por lo menos la apoye siguiendo el criterio del gobierno si bien el gobierno nos viene a decir poco más o menos

porque ya está previsto en el proyecto de ley de la administración pública vasca

y que esto ya lo que nosotros proponemos se encuentra superado por la realidad el caso es que si nosotros nos vamos a la realidad de la cámara

y casualmente se remite al parlamento vasco el once de octubre esa información que se tenía que haber remitido y que decía el punto nueve de este artículo

debía de recibir y digo casualmente porque lo que se nos ha enviado es esa información desde el segundo semestre de dos mil doce que incluye el dos mil trece entero y el primer semestre del dos mil catorce es decir tampoco este parlamento había recibido esa información

nosotros consideramos y siguiendo al propio señor consejero erkoreka ayer cuando nos presentaba y exponía

de que no hay mayor publicidad y transparencia que lo que se publica en el boletín oficial del país vasco pues nosotros siguiendo el criterio del señor consejero

se publiquen en el boletín oficial entre otras cosas porque así los propios ciudadanos

el control y habrá la transparencia suficiente y necesaria que incluso en este parlamento no hemos tenido nada más y muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna

la explicación está en el mismo texto de la propuesta que hacía

y por eso hemos votado a favor pinedo andrea zurea da txanda

empiezo vale vale es que parece que a nadie le interesa este punto baina guk baiezko bozka eman diogu

que se presentó se adquirió el compromiso de convertir la transparencia en un tema prioritario y transversal de toda la acción del gobierno particularmente en todo lo que implicara

damborenea jaunak esan eban no tengo claro que cuando en el caso de las subvenciones directas al gobierno se le dice que está mal y lo vuelve a hacer quiere decir que la gestión está mal o el gobierno

cuando se nos plantea a efectos de la transparencia que las subvenciones directas se tienen que publicar en el boletín oficial ya hay una ley que dice que se tienen que publicar que es la ley de subvenciones lo que no entiendo es que aunque no lo diga la ley de principios ya lo dice otra ley y se tiene que cumplir o estamos ante un incumplimiento de la obligación de una ley hori da gure legebiltzar taldeko

erkidegoan y según nuestra proposición esta proposición de ley presentada por el grupo popular viene a dar la razón a lo presentado a lo alegado por el gobierno vasco dado que en el que se manifestaba que los artículos cuarenta y nueve punto siete y cuarenta y nueve punto nueve de la ley de principios ordenadores

establecen que no será de aplicación a las subvenciones directas la publicidad de los acuerdos de concesión de las mismas y que lo que pueda establecer la ley de subvenciones no es de aplicación en la comunidad autónoma de euskadi en virtud de esa disposición adicional

gaur egun hemen eusko legebiltzarrean dagoena izapidetze bidean además en el calendario legislativo presentado por el gobierno vasco

y este será el texto adecuado para incluir tanto el contenido de esta propuesta como la de cualquier otra relacionada con las subvenciones